gipuzkoako patronalaren enpresarien elkarteak proposamen bat egiten du una propuesta la de adegi que va por el mismo camino que las propuestas realizadas por christine lagarde el lunes

realiza una propuesta de nuevo modelo de relaciones laborales en la que defiende la apertura de una tercera vía para superar el bloqueo en las relaciones laborales

de una interlocución directa con las personas en las empresas en dicha presentación está presente la consejera de desarrollo económico y competitividad

los primeros en responder a esta propuesta fueron los sindicatos todos se oponen a la propuesta en resumen

como una salvajada contra los derechos laborales porque pretenden individualizar las relaciones laborales para imponer a la baja las condiciones de trabajo no es una nueva idea sino muy vieja también se han realizado diferentes valoraciones por parte de las asociaciones de empresarios

y de confebask hemos visto como cebek la patronal vizcaína se desmarcaba de la propuesta de adegi

que la relación directa con los trabajadores y las trabajadoras ha existido siempre

pero las relaciones laborales no deben pivotar sobre ese modelo confebask

y lo entiende como una manera de superar el bloqueo de la negociación colectiva en gipuzkoa responsabilizando únicamente a la parte sindical de la situación

las diferentes opiniones valoraciones que se hacen desde los diferentes consejeros y consejeras del gobierno vasco lehen esan bezala arantza tapia sailburua

en todo caso no corresponde al gobierno ni explicar

y mi presencia como consejera en aquel acto como en tantos otros en los que acude tanto el lehendakari como cualquier otro consejero o consejera es la de y explicar la postura del gobierno no es ni la de atacar ni defender la propuesta que se planteaba allí sino la postura del gobierno puesto que como consejeros consejeras actuamos en esos casos

tal como se solicita expresamente quiero establecer de manera clara y nítida la propuesta y

alrededor de este tema que tiene el gobierno vasco lo voy a resumir en seis puntos en primer lugar no existen contradicciones en el gobierno sobre este tema

y nítida sí al diálogo social sí a los convenios colectivos y sí a la negociación en el ámbito de la empresa con el objetivo de adecuar los convenios sectoriales a la realidad de cada una de las empresas

asegurar además unas condiciones dignas de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras en segundo lugar en el ámbito de la negociación colectiva el gobierno persigue desbloquear la situación para que se recupere

interprofesionales sectoriales y en su caso de empresa la capacidad de ofrecer certidumbre y seguridad tanto al empresario

sin lugar a dudas las empresas necesitan tener un determinado margen de flexibilidad que les permita adaptarse a las coyunturas de mercado sean positivas

y los trabajadores necesitan tener una seguridad laboral que les permita desarrollar un proyecto vital digno ahora bien el gobierno es muy consciente

es un ámbito propio y exclusivo de los sindicatos y las organizaciones empresariales y que obliga a este gobierno y a cualquier otro a ser prudente y discreto

en tercer lugar desde el ámbito de lo que denominamos gestión avanzada

y uno de ellos es el de conseguir una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los convenios sectoriales a la situación específica y cambiante de todas y cada una de las empresas y por otra parte que sus trabajadores

de ese proyecto común llamado empresa la empresa es un proyecto común entre empresarios y trabajadores no es otra cosa para que les garantice un conocimiento más cercano a la realidad de la misma y este conocimiento en todos y cada uno de sus aspectos y sobre todo en lo relativos a la situación real que se atraviese en cada momento

más comprometidas con su futuro y además les aporte seguridad pero para ello

de otro tipo de herramientas herramientas que sin prescindir del convenio hagan más flexible su aplicación en función insisto de las necesidades reales

emprendan el camino de transitar de un modelo de relaciones laborales basado en la confrontación y el bloqueo

la transparencia la confianza y la participación de las personas y desde esta perspectiva el gobierno cree que son necesarias y por ello las va a favorecer estrategias que desarrollen la implicación de las personas en el proyecto colectivo denominado empresa

sindicatos y empresarios deben proceder con responsabilidad el gobierno puede facilitar ayudar pero la responsabilidad del acuerdo o no acuerdo

a través de la herramienta legal que existe en exclusiva para ello la negociación colectiva no existe otra la flexibilidad y adaptabilidad que el sistema requiere

los acuerdos en las empresas deben acordarse sin prescindir

y a su vez el bloqueo de la negociación colectiva no debe impedir la búsqueda de nuevos acuerdos y esta búsqueda se debe basar a nuestro juicio en el incremento de la confianza y de la transparencia en el seno de la empresa en quinto lugar quisiera añadir una precisión

todavía le queda alguna duda la individualización de las relaciones el que la negociación se traslade a nivel de cada trabajador no es una alternativa

ni deseable no es una alternativa a la negociación con los representantes de los trabajadores en las empresas no es una alternativa a la negociación colectiva y en sexto lugar quiero reivindicar el marco autónomo de relaciones laborales lo que está en el ámbito de la administración autónoma en materia laboral

es evidente y no está la legislación laboral en bloque tenemos competencia para ejecutar pero no para elaborar una legislación propia en materia laboral en este sentido quiero decir que aunque todavía no está en nuestras manos legislar este marco laboral aplicable a euskadi

de la reciente reforma laboral con la que no estamos de acuerdo

la firma de convenios en euskadi es la mejor manera de desactivar determinados aspectos negativos de la reciente reforma laboral y más allá de esta coyuntura

que integre de modo sostenible la flexibilidad laboral que requiere la empresa en todo momento con la seguridad laboral de quienes trabajan

no tenemos que olvidar los tres aspectos en este sistema vasco de relaciones laborales y quiero realizar por tanto

al diálogo social a la negociación y al pacto únicas herramientas de trabajo y como herramientas de primer orden para conseguir puntos de encuentro entre diferentes interlocutores interlocutores sociales y patronales y en definitiva contar con un nuevo marco estable de relaciones laborales y de negociación colectiva

y no podemos seguir ni un minuto más en la situación actual de confrontación y la base para ese cambio pasa por generar un sentimiento de compromiso

entre todas las personas de la organización solo mediante actitudes abiertas constructivas desde el respeto a los diferentes intereses porque son distintos y todos legítimos pero desde la asunción de ese proyecto compartido de empresa y de país

para después poderla repartir en un modelo de desarrollo humano sostenible que es el que estamos buscando eskerrik asko eskerrik asko tapia

horrela jasota agertzen da oker baldin banago esango didazue insta a las centrales sindicales al diálogo y a abandonar esquemas del pasado insta a los sindicatos quién le dio al lehendakari el portazo

o la patronal y a pesar de ello

dieciocho de enero adegi defiende una tercera vía en las relaciones laborales para superar el bloqueo veintiuno de enero deia

veinticinco de enero el correo crece la polémica con el gobierno por el modelo de relaciones laborales de adegi

uno de febrero deia adegi se queda sola con su propuesta

alavesa siete de febrero el correo adegi desmiente con rotundidad que quiera relaciones laborales individuales

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari eh bildu pedía

para que el propio gobierno vasco pudiera exponer la posición su propia posición y su propia valoración en relación a la propuesta realizada

el nuevo modelo de relaciones laborales planteado hace varias semanas

en un primer momento la señora tapia apoyó la iniciativa y el propio señor aburto días después llegó a decir

que compartía la filosofía planteada en esa propuesta de adegi de ahí la comparecencia solicitada quizás esta comparecencia hubiera encajado mejor

iniciativa parlamentaria quizás una pregunta quizás una interpelación pero en todo caso al tener este formato de comparecencia se entiende y entendemos que eh bildu además de querer conocer las opiniones del gobierno en relación a esta propuesta quiere también conocer las opiniones que tienen de partidos políticos en nuestra opinión lo importante era escuchar al gobierno también qué es lo que piensa en relación a esta propuesta y la señora tapia creo que lo ha explicado sabiendo en todo caso que esta no es una propuesta del gobierno no es

de ningún partido político sino que es una propuesta realizada por adegi es decir es su propuesta y conocemos efectivamente la propuesta realizada las claves en relación a los planteamientos realizados en esa propuesta

los convenios colectivos y la necesidad de alcanzar acuerdos se trata del nuevo modelo de relaciones laborales que propugna adegi que estaría basado en la confianza entre las partes y orientado a la necesidad de alcanzar acuerdos con las personas en el seno de las compañías para mejorar su competitividad que es una de las grandes obsesiones de la empresa o de las empresas mejorar

adegi señalaba que lo que pretendía ser una transición ordenada y progresiva en el tiempo hacia dicho modelo se ha convertido en una necesidad imperiosa como consecuencia sobre todo del nuevo escenario que se ha producido tras el siete de julio

presidente de la patronal guipuzcoana decía que estamos ante un cambio de época que requiere una transformación de las relaciones laborales transitando hacia una interlocución directa con las personas de nuestras empresas sin olvidar el cumplimiento de las obligaciones con los representantes legales de los trabajadores la patronal

y que recoge una serie de recomendaciones prácticas el nuevo modelo centra en la empresa la necesidad de alcanzar acuerdos con las personas para mejorar la competitividad esa sería la idea troncal de lo que pretende ser una especie de revolución de las relaciones

que está inspirada en determinadas experiencias prácticas novedosas que ya han implantado algunas empresas guipuzcoanas se trataría según se dice de un modelo dinámico abierto e inclusivo en el que adegi propone que las compañías sean transparentes den información

e incluso en los resultados la patronal recomienda a las empresas que conozcan

pone a su disposición incide en que para mejorar la competitividad es deseable aumentar la productividad y contener o variabilizar los costes salariales

una revisión anual de los salarios que contemple la evolución de la productividad estableciendo sistemas de retribución variable que incluyan incentivos

no supone rebajar sueldos ni menor coste laboral

beneficia a todos en relación a la negociación colectiva aboga por respetar los derechos adquiridos por los trabajadores pero recuerda que las condiciones recogidas en un convenio colectivo no constituyen derechos adquiridos y así mismo propugna revisar el histórico de los pactos de la empresa los contratos de trabajo y la estructura salarial de las nóminas para adoptar una decisión coherente y razonada que garantice la competitividad de la compañía en fin todo esto y algunas cosas más es lo que se propone en ese

recibió en su momento y sigue recibiendo multitud de críticas de todos los sindicatos de la mayoría de los partidos políticos y en un momento también del propio consejero aburto que llamó acertadamente a adegi a reflexionar sobre la propuesta planteada vistas las críticas recibidas y nosotros también hacemos un llamamiento a adegi a reflexionar puesto que efectivamente su propuesta

prácticamente ningún apoyo nosotros tenemos claro que las empresas como cualquiera de nosotros se aprovechan de las leyes que les benefician

y en nuestra opinión lo que se trata es de cambiar leyes injustas y sin ir más lejos la última reforma laboral es una de esas medidas injustas que habría que cambiar hemos definido aquí y en el congreso en innumerables ocasiones

adjetivos que merece esta reforma laboral del gobierno de españa la hemos calificado de regresiva de injusta de abusiva

una reforma laboral que debilita gravemente la posición de los trabajadores y que precariza las condiciones laborales de los trabajadores y que además según estamos comprobando está

resultados claramente nefastos no solo todo lo anterior señalado sino también el crecimiento del empleo temporal el crecimiento del empleo parcial el crecimiento del empleo precario y la disminución del sueldo de los trabajadores y ciertamente

condiciones laborales cada día más penosas

en relación a la creación de empleo precario en este caso a la creación de empleo

a la disminución del sueldo de los trabajadores son muchos datos los que tenemos encima de la mesa y que todos ustedes conocen son datos que demuestran claramente

laboral el paro sigue en niveles absolutamente inaceptables y el empleo que se crea es temporal y precario nosotros presentamos en su momento nuestra propia alternativa planteada en el congreso de los diputados que incluía además la introducción del contrato único indefinido con indemnización creciente en la línea de lo que se hace

en el mercado laboral español lo cierto es que días después de esta polémica adegi

que buscara individualizar las relaciones laborales nuestra propuesta decía

se abran a compartir la información de la empresa con los trabajadores de modo que se puedan crear espacios de transparencia participación

en las compañías porque eso redundará en un clima de mayor confianza mutua que facilitará acuerdos colectivos en la empresa y comportará a su vez mejoras competitivas como las que

ni de imponer condiciones individuales a nadie ni de suplantar o la negociación colectiva bien nosotros esperamos que estas correcciones sean ciertas lo cierto es que se habla y se insiste mucho en la necesidad de compartir la información

de ganar en información de apoyar la participación de los trabajadores

lo que pasa es que no podemos olvidar el papel fundamental de los sindicatos tampoco el de los empresarios pero especialmente el de los sindicatos que es la negociación colectiva en este punto habría que romper y queremos romper una lanza en favor de los sindicatos ahora vilipendiados por algunos su labor ha sido históricamente extraordinaria y más allá de que deban modernizarse o adecuarse a los nuevos tiempos

no podemos olvidar esa labor extraordinaria que han venido realizando en nuestra opinión los sindicatos deben abogar negociación abandonar la línea de la confrontación abandonar la línea y el lenguaje de la lucha de clases especialmente por algún sindicato abandonar el bloqueo y abogar por la negociación para defender de la mejor manera posible las condiciones laborales de los trabajadores que al fin y al cabo es su labor y primordial lo cierto es que durante décadas patronal y sindicatos han mantenido en gipuzkoa un nivel de interlocución que ha permitido el tejido empresarial superar crisis

más reducidas esa es la vía en nuestra opinión la negociación

descartando en todo caso la aplicación unilateral de las condiciones laborales la patronal insiste permanentemente en la necesidad de ganar en competitividad insiste absolutamente en este hecho y nosotros lo que queremos también dejar claro y decir es que es imposible

sea competitiva sin tener unos empleados plenamente identificados con la empresa y bien tratados involucrados y con unas condiciones laborales estables y dignas unos empleados corresponsables y partícipes con las decisiones de la empresa una empresa que quiera ser competitiva deberá

voy terminando competir renovarse observar y aprender

modernizarse mejorar la productividad e introducir también cierta flexibilidad pero sin que ello suponga la aplicación unilateral de las condiciones por tanto y termino empresarios y trabajadores se necesitan mutuamente y es imprescindible que compartan una mayor información más transparencia que exista más participación y colaboración de los trabajadores que exista una mayor confianza y también es indispensable la negociación colectiva

incluyendo condiciones dignas para todos los trabajadores y la mayor estabilidad posible pensamos

para los trabajadores para las empresas y para el conjunto de la sociedad gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta egun on guztioi buenos días lehendakari buenos días señora consejera

usted cuál es la postura en su primera intervención la postura del gobierno

este grupo está de acuerdo en primer lugar creo que conviene centrar el debate y aclarar algunas cuestiones que aunque ya se han hecho referencia aquí yo también no quiero dejar de hacerlo que cuestiones que han podido dar lugar a confusiones e interpretaciones erróneas originadas por el documento inicial adegi es verdad que presentó el documento guía para un nuevo modelo de relaciones laborales

otro que se denominaba guía para una nueva cultura de empresa y que omite el párrafo que expresaba literalmente la individualización de las relaciones laborales

expresó públicamente que la negociación colectiva es y seguirá siendo una de las señas de identidad de la patronal guipuzcoana y que no se trata de negociar individualmente y de imponer condiciones individuales ni de suplantar la negociación colectiva

que ofrece la reforma laboral mediante una negociación colaborativa por lo tanto desde este grupo político no tenemos por qué poner en duda las intenciones expresadas por la propia patronal en el sentido

para alcanzar acuerdos entre la parte sindical y empresarial también es evidente que nosotros creemos

pone de manifiesto la propia adegi por un modelo evolucionado y moderno

y un buen ejemplo de esto aunque algunos la denoten continuamente es el recogido en la reforma laboral

de mariano rajoy un modelo que apuesta claramente por la negociación colectiva y los convenios colectivos a través de una visión evolucionada moderna y adaptada al contexto presente pero que tiene como objetivo fijar las bases para coyunturas futuras la reforma garantiza un marco de relaciones laborales donde los convenios colectivos

el objetivo primordial pero ofreciendo instrumentos para que estos convenios y esta negociación pueda dotarse de una mayor flexibilidad la reforma laboral en ningún caso recoge la posibilidad de establecer acuerdos individualizados lo que sí permite es el objetivo de conseguir un acuerdo colectivo pueda tener un camino

en el que en muchas ocasiones y por la rigidez del propio sistema era utilizado como fórmula de bloqueo tal y como ha dicho aquí la propia

porque no nos llamemos a engaño la fórmula del convenio empresarial que es la fórmula más flexibilizada de negociación colectiva que recoge la reforma laboral no se adentra en ningún momento y no puede entenderse

por ello desde este grupo queremos dejar claro que apostamos por la negociación colectiva y creemos firmemente en los acuerdos entre las partes

pero hay que dejar igualmente claro que la legislación debe ofrecer mecanismos para evitar y sortear a quienes no pretenden llegar a acuerdos sino que simplemente lo que pretenden negociaciones sine die y bloqueos perpetuos amparados en una legislación que favorecía

y en las posiciones la reforma laboral lo que ha conseguido es romper el desequilibrio que existía hasta ahora debido a la inflexibilidad y la rigidez de la legislación y que era aprovechado por posiciones maximalistas para mantener condiciones laborales que en la coyuntura actual eran

fueran absolutamente inviables por lo tanto y queremos dejarlo

apuesta por acuerdos y negociaciones flexibles en armonía con el concepto de

y en ese contexto está la propuesta de adegi la crisis ha tenido y tiene efectos tremendamente negativos para los ciudadanos y en definitiva para el conjunto del país

determinados planteamientos enfoques y parámetros también

es evidente como han dicho otros grupos aquí que estamos ante un cambio de ciclo

a un cambio cuasi de época en el marco de las relaciones laborales y empresariales y en ese sentido va la propuesta no podemos permanecer anclados en modelos caducos

y comprimen sino que lo que necesitamos es un marco flexible ágil y dinámico que ofrezca respuestas y soluciones que favorezcan la viabilidad empresarial y por tanto el mantenimiento del empleo necesitamos un cambio de cultura laboral y empresarial

donde tanto empresarios directivos y trabajadores den muestras inequívocas de su compromiso

necesitamos una cultura que rompa los clichés y las barreras existentes y que considere

porque hay que tener claro una cuestión sin trabajadores no hay empresa pero sin empresas no hay trabajadores por lo tanto

y desde este grupo consideramos que en aras a conseguir ese objetivo el gobierno vasco tiene la misión de liderar una nueva forma de entender la cultura laboral y empresarial

alta conflictividad que vivimos en euskadi del que usted ha dado las cifras no se ha conseguido necesitamos una nueva cultura que evite el cierre de las mil doscientos dieciséis empresas como ocurrió en el pasado ejercicio

el gobierno vasco tiene la obligación en primer lugar de preservar para posteriormente fortalecer y revitalizar el tejido empresarial vasco es necesario un gobierno que lidere la mejora de la actividad en euskadi cuya tasa en el pasado ejercicio

siete por debajo de las islas baleares ya hemos sido superados incluso por comunidades como ceuta y melilla tasas de actividad que han descendido en más de dos puntos desde el año dos mil once pasando de cincuenta y ocho coma cincuenta y seis al actual cincuenta y seis coma setenta y tres y este es el termómetro real del empleo

y evitar fugas que favorezca la desinversión y para ello euskadi debe presentarse como un territorio atractivo para invertir no podemos permitirnos el lujo

en territorios cercanos simplemente porque nuestros vecinos y sus gobiernos les brindan mayores y mejores oportunidades para el desarrollo de sus proyectos empresariales

para trasladarse a otros puntos de españa y una de las causas de todo lo anterior son costes laborales que tenemos en euskadi las empresas vascas tienen que competir en un mercado y en un mundo globalizado y es evidente que nuestras empresas deben dar un salto cualitativo

y de conocimiento porque es muy difícil y ello es muy difícil con los costes laborales actuales

debe pasar por generar clímax y espacios de entendimiento y marcos de confianza que permitan solucionar la conflictividad existente en este momento y que contribuya a reactivar el tejido empresarial vasco necesitamos un modelo laboral al servicio de la eficiencia y de la competitividad de nuestras empresas tienen que competir en un mercado único internacional y para ello necesitamos realizar un escáner y una radiografía socio económica actual que nos permita adoptar medidas valientes que desarrollen la modernización de nuestro modelo laboral y empresarial porque urge

urge ofrecer una respuesta a los miles de vascos que han decidido emigrar a otros nichos de oportunidades laborales para que puedan regresar a euskadi urge ofrecer una respuesta ágil a esos seis de cada diez jóvenes vascos

un proyecto laboral y por extensión su proyecto vital fuera de euskadi y urge dar una respuesta al conjunto del tejido productivo vasco para reinvertir

el gobierno de españa ha adoptado y sentado las bases para la modernización y la recuperación económica es el turno del gobierno vasco que no puede permanecer agazapado con la esperanza de que la recuperación de la economía española arrastre la economía vasca

lidere y colabore desde la lealtad institucional con el gobierno de españa para que el nuevo modelo de relaciones laborales contribuya a poner fin al principal reto institucional al que nos enfrentamos

hablamos de lo que piensa el gobierno del documento de adegi realmente a mí se me presenta difícil iniciar esta exposición

porque efectivamente para conocer en profundidad la opinión del gobierno habría que leer previamente el documento de adegi

el lehendakari que ha hablado por boca de la consejera nos decía en un foro conocido que el ejecutivo se ve sometido en el día a día a una gran presión en demanda de acciones urgentes y respuestas inmediatas para lo que se extrema en las posturas de oposición

se utiliza la vida parlamentaria como ariete de desgaste político y del gobierno se tensan los posicionamientos socio económicos se extreman las posturas críticas y los planteamientos demagógicos

no sé cómo dar una opinión sobre lo que opina el gobierno sin plantearme

políticos el documento de adegi efectivamente hablaba de una guía para unas relaciones laborales sin embargo adegi en pocos días hizo esa reflexión hizo esa reflexión como la señora llanos a denominado en la que llama nueva cultura de empresa y efectivamente en todo ese documento lo único que se ha hecho ha sido suprimir el apartado que hablaba como ha dicho la señora llanos

aquí el párrafo decía lo siguiente la individualización de las relaciones laborales puede luego posibilitar alcanzar acuerdos colectivos es una herramienta legal que tienes que trabajar

por ello no te limites a utilizar las cláusulas contenidas en el modelo oficial claro esto se ha suprimido en el resumen ejecutivo

si el resto del documento sigue igual y se ha suprimido ese párrafo que era claramente pues en fin

pero parece ser que la filosofía que subyace en el resto del documento no se ha alterado por lo tanto

la intención sin embargo tampoco nos parece que sea una intención

lo cierto es que entre la autonomía de la voluntad colectiva y la autonomía particular no necesariamente tiene que haber colisión a todo esto

de mil novecientos ochenta y cinco que la negociación colectiva no puede anular la autonomía individual pues esta

personal ha de contar con un margen de actuación incluso en unos ámbitos como los de la empresa en los que exigencias de índole económica técnica o productiva reclaman una conformación colectiva de condiciones uniformes y segundo

pues ello equivaldría a negar toda virtualidad a la negociación colectiva en contra de la precisión constitucional que la configura como un instrumento esencial para la ordenación de las relaciones de trabajo

en cuya naturaleza está el predominio de la voluntad colectiva sobre la individual qué quiere decir

la clase empresarial puede tener un interés en buscar por vía de incentivos y de estímulos el trato personalizado pero claro aquí todos estamos defendiendo la negociación colectiva incluido el partido popular que emprende una reforma que se la carga

proponente de esta comparecencia también está a favor de la negociación colectiva pero me gustaría saber porque todos tenemos algo que decir en este tema cuál ha sido el papel

las fuerzas políticas y de las centrales sindicales afines en este asunto porque la negociación colectiva como se suele decir

se murió decía el lehendakari cuando lo citaba que le apremiamos con urgencia pero verá en el dieciocho de julio bonita fecha este parlamento instaba al gobierno a mantener la iniciativa en favor de un diálogo social entre las organizaciones sindicales y las patronales

una dualidad en las condiciones de los trabajadores contratados antes y después del fin de los convenios hombre

habla de que el gobierno está a favor del diálogo social fíjese en qué fechas estamos y no se ha llevado a cabo ninguna acción decidida porque todo han sido sabemos las razones sobra decirlo pero es que realmente si se creen algo hay que llevarlo a término por encima de esos imponderables porque esos imponderables no van a remitir

por otra parte la patronal plantea una cuestión que también es un reduccionismo y que concuerda precisamente con lo que nos decían los altos dignatarios que estos días se reunían en bilbao

los costes laborales la competitividad pero vamos a ver la competitividad relación entre los costes y la productividad realmente la clase empresarial a mí me gustaría que así fuera está verdaderamente decidida

la variabilidad de las retribuciones tenga que ver con la productividad en europa en los últimos veinticinco años los salarios han aumentado la mitad exactamente que la productividad

no es verdad porque la productividad no solo tiene que ver con los costes salariales o las políticas

también tiene que ver con la política de inversiones con las condiciones de trabajo con muchas otras cosas tiene que ver la productividad y realmente los empresarios están dispuestos

esa idea de transparencia porque desde luego eso sí que daría pie a un marco de relaciones laborales nuevo distinto quizás basado más en el consenso y en el diálogo y no en la confrontación pero es que esa

requiere dos cosas que yo creo que los empresarios en general no estarían dispuestos en primer lugar la transparencia significa enseñar las tripas de la empresa

y en segundo lugar da a los trabajadores el poder de definir cuáles son los factores de productividad y eso tampoco es un poder que los empresarios estén dispuestos

sin embargo creyendo que efectivamente hacen falta nuevos modelos

de que eso se podría favorecer pero cómo se puede favorecer esa productividad hoy en día en la que décimos que intervienen otros elementos si no hay diálogo social

es que aquí hablamos ya no de adegi hablamos del gobierno y el gobierno ha dicho aquí hace unos minutos que está a favor del diálogo social y nosotros no lo vemos señora tapia lo que vemos es que el gobierno sigue digamos en su puesto

decida cambiar de posición para entonces dar los pasos y eso no puede ser así señora tapia no puede ser así de ninguna manera por lo tanto

con los trabajadores personalizada será siempre que haya una negociación colectiva como telón de fondo y eso es

a lo que no se está conduciendo desde el gobierno porque es verdad que en la negociación colectiva intervienen dos agentes económicos y sociales

pero el gobierno tiene que auspiciar tiene que promover tiene que crear las condiciones es que lo que vemos es que además de los lamentos un gobierno muy delicado por cierto porque claro en fin echar mano de este tipo de declaraciones no sé qué papel esperan que tenga el parlamento o qué papel tiene que tener la oposición una oposición low cost no

establecieron que la oposición sería mucho más numerosa y por lo tanto tiene mayor intensidad en su ejercicio pero reprochar que la oposición no le deja trabajar al gobierno cuando lo que vemos en este tema en concreto es una inactividad total

pues no adegi hace lo que le parece efectivamente

rectificación pero de un párrafo la filosofía de momento no parece que haya desaparecido porque solo se suprime un párrafo del resumen ejecutivo el resto del documento

es idéntico en su integridad por lo tanto eso también habría que ver si realmente una rectificación en profundidad o simplemente un mero maquillaje en el resumen ejecutivo para que no sea motivo de discordia pero si realmente el gobierno quiere llevar por el camino de la negociación colectiva del diálogo de la concertación

porque claro los datos que estamos recibiendo sobre el desempleo tampoco

en nuestro favor en estos momentos lo que requieren estas situaciones es una mayor decisión se lo he dicho muchas veces a su gobierno mayor resolución mayor determinación y
poner a los asuntos lo demás los lamentos la inactividad y el compás de espera no nos lleva a ninguna parte eskerrik asko itxaso jauna

hitz egiten duenak la creación y mejora de empleo en euskadi debe acompañarse de la consolidación de un sistema vasco de relaciones laborales que facilite el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresas la cultura del diálogo y negociación permanentes entre los agentes sociales

en innumerables ocasiones pero que insistimos mientras no haya un pronunciamiento en contra del tribunal constitucional es de obligado cumplimiento como muy bien saben sus señorías

posible los efectos que la citada reforma conlleva para la negociación colectiva

múltiples reuniones con representantes sindicales patronal agentes sociales y económicos para intentar llegar a acuerdos a fin de evitar menoscabar los logros

han conseguido los trabajadores y trabajadoras la labor de intermediación del gobierno vasco ha sido permanente

el gobierno vasco con el lehendakari urkullu a la cabeza intentó la mediación entre patronal y sindicatos favorecer el diálogo entre ambas partes ante la inminente llegada del día siete de julio del año pasado fecha en la que finalizaba

tanto la patronal como los sindicatos ugt comisiones obreras y lab a instancias del gobierno vasco se reunieron aunque por diversos motivos que no vienen al caso traer a colación no fue posible alcanzar ningún acuerdo ni tan siquiera acudió a la llamada del gobierno ni se sentó a dialogar bakoitzak jakingo du bere erantzukizuna gai honetan zein den

está y estará dispuesto a intermediar a facilitar el clima para que las partes legitimadas para establecer las condiciones de trabajo que son las asociaciones empresariales y sindicales avancen en la consecución de acuerdos compartimos la necesidad de llegar a acuerdos creemos imprescindible

a todos los problemas derivados de la crisis económica y de la falta de empleo en este momento existe un clima de desconfianza total entre patronal y sindicatos reiteramos la necesidad de diálogo de todos sindicatos empresarios y los diferentes agentes sociales y económicos todos

como ha dicho la consejera euskadi tiene unos niveles de beligerancia y conflictividad laboral que no se corresponden con el tipo de sociedad desarrollada que hemos ido construyendo entre todos

errepikatuko dicha conflictividad que está destruyendo alejando inversiones espantando posibles nuevas implantaciones industriales y empresariales baina parteren batek ez duenean hitz egin nahi ez doanean

eta bai aburto sailburuek a nuestro juicio el modelo actual está agotado no hay diálogo entre patronal y la mayoría sindical de este país pero hay que seguir avanzando las empresas y los trabajadores y trabajadoras necesitan seguridad necesitan llegar a acuerdos

para ello es necesario retomar cauces de comunicación permanentes adaptados a la realidad y situación actuales el gobierno

son patronal y sindicatos trabaja para recuperar la certidumbre y seguridad tan necesarias para las empresas como para los trabajadores y el compromiso del gobierno es la creación de las condiciones y los estímulos precisos para la generación de un clima y esperanza que permita a patronal y representantes de los trabajadores

las mejores condiciones para ambos adaptándolas a la situación actual lan harremanetan konfrontazio eta blokeo modelo batetik komunikazio

beharrezkoa iruditzen zaigu y el gobierno puede ayudar a intermediar a sentarse con las partes legitimadas para la negociación colectiva empresas y sindicatos y facilitar el diálogo entre ambas hacer

entre comillas también procurar que avancen en lograr acuerdos beneficiosos tanto para las empresas como para los trabajadores y trabajadoras

y menos crispado legebiltzarreko talde gehienak

y me alegro en general de que todos los grupos que han hablado en esta tribuna estamos de acuerdo

que es que la empresa es de los empresarios y de los trabajadores y que entre todos hay que buscar un modelo distinto un modelo más avanzado y un modelo

y a partir de esta premisa creo que es la forma en la que se puede conseguir un acuerdo importante

seguro pero basado en esa confianza y transparencia en este momento estamos en una situación de bloqueo terrible precisamente por esa falta de confianza

y para llegar a un acuerdo todos sabemos que cada uno tiene que dejar parte de suposición para conseguir un acuerdo por el bien común y esa es la parte más importante

de obsesión pero la competitividad sí es importante y creo que estamos de acuerdo porque esa es la única forma en la que vamos a tener un sistema económico suficientemente importante como para mantener la garantía social de la que nos hemos dotado

cogestionar en muchas cosas y tomar decisiones compartidas no hay otro camino en eso estamos completamente de acuerdo y algunas de las empresas de las que usted hablaba también a las que adegi hace referencia

precisamente han implantado ese modelo unas empresas por cierto

ni de su ámbito sindical ni en las que no existe convenio colectivo justo lo contrario en cada una de ellas en todas y cada una existe un convenio colectivo negociado entre patronal y sindicatos pero eso no es óbice para que exista un clima de confianza de transparencia y de trabajo de forma conjunta

facilita la constitución y la puesta en marcha de convenios colectivos no podemos evitar o no podemos dejar de hacer cosas porque hay algunas partes que se sientan en el bloqueo absoluto y el no hacer nada no podemos sentarnos y esperar

este nuevo modelo algo en lo que el gobierno también trabaja desde luego nos va a llevar a un cambio de paradigma en el que decía

el único canal de comunicación entre empresarios y trabajadores son una parte importante en la negociación colectiva por supuesto y no podemos huir de ellos pero no deben ser el único canal de comunicación

el establecimiento de convenios colectivos el establecimiento de nuevos objetivos en la empresa y las empresas son en general más competitivas y mucho más productivas no podemos olvidarnos de ello desde el gobierno trabajamos en dos departamentos distintos una parte en las relaciones laborales y por nuestra parte en ese nuevo modelo de gestión más innovadora

pero ello no es suficiente trabajamos también en la implantación de un sistema más innovador más transparente más de confianza y

para que esto sea una realidad en todas y cada una de las empresas del territorio del territorio euskadi me refiero en este caso lo único que no estamos de acuerdo señora llanos evidentemente en la reforma laboral emprendida por el gobierno del señor rajoy y ahí no estamos agazapados ni es que no somos leales simplemente décimos no es el modelo que nosotros propugnamos queremos un modelo propio en euskadi y lo décimos con toda la lealtad con la máxima lealtad queremos otro modelo y creemos que es posible

documento pues yo no le puedo decir cuáles son sus intenciones pero desde luego lo que sí le puedo decir es que al dialogo social sí lo comentaba previamente por supuesto pero un dialogo social en el que estemos los máximos

el máximo número de representantes eso no quiere decir que el gobierno está parado el gobierno está trabajando activamente para sentar en esa mesa de diálogo social al máximo número de agentes porque no sentando a la mayoría sindical tampoco se consigue algo que después vaya a ser implantado en todas las empresas no es inactividad esa actividad de otra manera

y desde luego la patronal busca la competitividad sí

en muchas ocasiones y usted hacía referencia precisamente al foro global del lunes

nada sospechosas de no tener empresarios importantes ni de ser empresas realmente competitivas y productivas como son gestamp y sener en este momento hablaban públicamente el lunes de que los costes laborales la rebaja de los costes laborales no son el medio de conseguir mayor competitividad y mayor productividad estamos de acuerdo y ese es el camino

ese máximo diálogo y una implantación clara dentro de nuestras empresas tenemos que colaborar codefinir y confiar sobre todo unos en los otros de otro modo va a ser imposible un dialogo social porque estamos buscando entre todos decíamos un modelo nuevo lan eredu

gelditu gabe entre el dos mil ocho y el dos mil doce la pérdida salarial media en la comunidad autónoma vasca hasta el dos mil doce fue de siete coma quince por ciento y en nafarroa de nueve coma quince por ciento

por lo tanto seguramente los porcentajes hayan subido eta nik uste dut horrekin lotuta

sí gracias presidenta de manera muy breve porque efectivamente la señora consejera

cuando me refería a la obsesión de las empresas por alcanzar la mayor competitividad posible quizás me he expresado mal evidentemente es un objetivo

lo más competitivas posibles y a nosotros nos parece correcto que

ese objetivo como no podía ser de otra manera el tema es cómo se pretende alcanzar esa competitividad y en ocasiones observamos que hay una determinada por parte de determinadas corrientes ideológicas o incluso por parte de determinadas empresas en tratar de alcanzar esa competitividad fijándose únicamente en las condiciones laborales o salariales de los trabajadores y esto a nosotros nos parece una muy mala idea y una grave equivocación y evidentemente la competitividad

como de los trabajadores pero nosotros pensamos que la competitividad no se va a alcanzar por esa vía y que efectivamente es una ingenuidad plantearse se alcanzará una mayor competitividad digamos que empeorando las condiciones salariales de los trabajadores o atacando sus derechos fundamentales o sus derechos

y yo decía que es absolutamente fundamental para ganar

que los empleados estén plenamente identificados con la empresa que estén bien tratados que se respeten sus condiciones salariales y laborales

que tengan unas condiciones laborales dignas y estables creo que esa es la mejor manera de alcanzar la mayor competitividad para los resultados de las empresas para mejorar los resultados también de los propios trabajadores y para salir de esta situación cuanto antes interesa por lo tanto a las empresas

pero el asunto es cómo se consigue esa mayor competitividad y yo insistía en el primer turno en que en nuestra opinión una empresa que quiera se competitiva más competitiva

a la realidad del mercado deberá innovar deberá investigar deberá competir deberá modernizarse deberá

pero que en todo caso sin que ello suponga la aplicación unilateral de las condiciones

no ha quedado suficientemente claro competitividad sí pero no a costa de las condiciones laborales de los trabajadores interesa también

que los trabajadores mantengan esas condiciones tengan un empleo digno estable y de calidad interesa a las empresas interesa a los trabajadores interesa a todos

bien después de lo que estamos oyendo aquí

que parece que todo el mundo tiene claro el concepto de flexiseguridad que es un concepto que se utiliza en europa desde hace mucho tiempo

sin embargo para otras cuando existen modelos como este que lo que hace es combinar como bien decía la consejera la flexibilidad con la seguridad

y yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí en que tiene que el modelo es necesario un nuevo modelo

además en el que no se tenga la empresa

dos todos absolutamente enfrentados siempre sino como dos partes de un mismo todo

y en ocasiones poca voluntad de acuerdo se demuestra cuando lo que existe es el bloqueo permanente

el establecer posturas absolutamente maximalistas en no reconocer que la coyuntura ha cambiado

con una coyuntura actual como digo que nada tiene que ver con la de hace unos años eso no es mostrar una voluntad de acordar yo creo que en ese sentido

a plantear un modelo nuevo un modelo diferente y como ya decía en mi primera intervención

lo que quería era eso favorecer la negociación colectiva pero evitando los bloqueos evitar ese bloqueo permanente evitar que

pues no fuera posible llegar a acuerdos y claro que la competitividad interesa

nos tiene que interesar a los vascos porque que una empresa sea competitiva significa que va a ser absolutamente más rentable es que es así y precisamente hay dos elementos

y otro son los costes laborales pero es que los costes laborales también hay que ponerlos encima de la mesa es que hay determinados concepto

porque adegi diga que es necesario tener en cuenta los costes laborales y que hay que hacer una reflexión y una revisión del binomio entre costes y jornada laboral

porque en euskadi tenemos los costes laborales más altos de toda españa y el menor número de horas efectivas trabajadas tenemos un coste laboral por hora efectiva trabajada de ciento veinticinco coma nueve

y eso hay que ponerlo encima de la mesa si queremos que nuestras empresas sean competitivas hay que ponerlos encima de la mesa lo que no se puede hacer es quien pone algo que es una realidad encima de la mesa

criminalización y nosotros estamos de acuerdo con usted señora consejera en que hay que actuar en que uno no puede quedarse con los brazos cruzados mirando

adaptarse a las coyunturas actuales uno quedarse ahí parado

lo que también pedimos del gobierno vasco lo que pedimos es precisamente es

marco propio de relaciones laborales qué es lo que no le gusta del marco que sea un marco del gobierno español o la reforma laboral o no le gusta su contenido porque alguno de los conceptos que usted ha dicho en sus dos intervenciones sobre la flexibilidad sobre la necesidad de adaptación a la coyuntura sobre

la reforma laboral en muchas cuestiones coinciden con la reforma laboral entonces yo creo que tampoco

aquí que la normativa está para cumplirse pero yo creo que hombre

euskadi va a salir de la crisis en parte va a salir porque medidas tomadas por el gobierno de españa van a servir para que salga de la crisis y lo que no puede ser es eso es

pero no querer estar a las duras porque es verdad que hay que actuar pero a veces hay que tomar medidas valientes hay que poner conceptos encima de la mesa y eso no significa ni ir en contra de la negociación colectiva ni ir en contra de los derechos de los trabajadores de sus condiciones de que tienen que tener unas condiciones laborales sino que significa que estamos en una situación distinta y que eso requiere soluciones distintas nada más muchas gracias

por si no ha quedado claro en la anterior intervención señalar solemnemente que el grupo parlamentario socialista

en el uso y en el ejercicio de sus derechos lo que pasa es que para nosotros es harto sorprendente que posiciones

representan intereses tan distintos como los sindicales y los empresariales convergen en una idea nuclear y es vamos a potenciar la negociación en las empresas

defendemos la negociación colectiva de verdad creemos en ella porque no es verdad que esté del todo bloqueada

por lo tanto no está del todo bloqueada hay algo de vida ahí luego es posible ampliar también ese espectro

el nivel de cobertura de los asalariados con convenios fíjense fíjense algún objetivo alguno

claro la confianza la confianza es lo que todo el mundo quiere rescatar

claro usted cree señora consejera que si los empresarios haciendo por supuesto uso legal

haciendo uso de esos instrumentos se podrá recuperar la confianza por parte de los trabajadores es difícil es difícil es decir sí

las cosas que se están haciendo pero al mismo tiempo pedir que se recupere la confianza esto es la cuadratura del círculo

y aunque los datos no concuerdan eso lo que revela y usted también lo ha dicho es que efectivamente la confrontación ha aumentado

claramente porque la reforma laboral aboca a todo eso aboca a todo eso y no hay mire yo no tengo posibilidades de estar con empresas de ese porte pero estoy con otras y lo que me dicen es el recibo de la luz

respecto del recibo anterior hemos perdido competitividad de golpe porque es que aquí cuando hablamos de competitividad y también de una forma yo creo que tendenciosa porque si no eso requeriría clarificación el documento de adegi termina por hablar

competitividad luego costes salariales es que la competitividad está en los precios finales

solo es posible con ajustes de salarios y devaluaciones de los mismos es que la palabra competitividad que ya todos los debates parece que está asociada única y exclusivamente a la pérdida de poder salarial y cuando se dice que lo quieren vincular a la productividad sí

pero vamos a ver si es verdad porque realmente cuando se vincula un salario a la productividad

y yo creo que todavía esa cultura está lejos nosotros la deseamos porque efectivamente demostraría un grado de

y de sentido común colectivo importante pero eso a día de hoy no es posible

lo que nosotros le planteamos al gobierno de nuevo una vez más reiteradamente hasta la saciedad es promuevan el diálogo social fomenten la negociación colectiva

pero ya vemos que aquí se ha producido una situación paradójica y diabólica una central sindical y unos empresarios que buscan justamente lo mismo que la negociación colectiva sea un recuerdo del pasado a los acuerdos de empresa y además subrepticiamente a través de la individualización porque aunque se haya suprimido el párrafo la filosofía subyace y eso hay que ir desterrándolo en todo caso solo tendrá sentido si es para mejorar

norma más favorable y condición más ventajosa a partir de unas condiciones generales que pueda haber políticas de incentivos políticas de estímulo para mejorar la implicación de los trabajadores en la empresa pero mientras tanto realmente

la propuesta que les hago busquen un objetivo porcentual para aumentar el nivel de cobertura de los asalariados con convenio

lan erreformaren alde no ha servido para crear empleo a pesar de que algunos grupos han puesto en valor

su bonanza no ha servido para crear empleo los datos

sea una ley y no sea recurrida no sea anulada por el tribunal constitucional ante el que ha sido recurrida es de obligado cumplimiento para todos y desde luego este grupo nunca ha favorecido la insumisión a las leyes en vigor y este gobierno

estamos de acuerdo en que cuando las leyes son injustas hay que cambiarlas pero mientras insistimos nos obliga y ahí donde hemos podido hemos insistido en que habrá que modificar esta ley para evitar sus consecuencias nefastas

por la negociación colectiva para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras y abandonar la confrontación totalmente de acuerdo los empresarios y trabajadores se necesitan mutuamente se ha dicho y estamos de acuerdo que

los empresarios necesitan a los trabajadores y los trabajadores necesitan a la empresa nosotros también euzko abertzaleak cree en la negociación colectiva y en la importancia

la semana que viene volveremos a discutir en este parlamento puesto que hay una iniciativa al respecto por lo tanto

hablar del diálogo social en concreto en el día de hoy para finalizar nosotros entendemos euzko abertzaleak entiende que es necesario desbloquear la negociación colectiva y para ello es totalmente necesario el diálogo entre las partes los agentes como hemos dicho hoy en un montón de ocasiones las empresas y los sindicatos y el gobierno está dispuesto a arbitrar a convocar a intermediar pero los que tienen

y las empresas y el gobierno dispuesto a ayudar en todo caso hay que adaptarse a la nueva situación una mayor confianza mayor

a nuestro juicio también empresarios y trabajadores forman un conjunto que es la empresa pero en la que ambos son totalmente necesarios

sí al diálogo social sí a los convenios colectivos y sí a la negociación en el ámbito de la empresa para adecuar los convenios sectoriales a la realidad de la propia empresa

gracias señora presidenta señorías la moción que nos presenta el grupo eh bildu hace referencia al proyecto decreto de modificación del decreto ciento veintiséis barra dos mil doce

para ajustar su contenido a los requerimientos de la unión europea a fin de garantizar el cumplimiento del artículo treinta y cuatro del tratado de funcionamiento de la unión europea

el objetivo de este decreto no es otro que el de proteger poner en valor y diferenciar los productos artesanos del país vasco

autónoma no puedan acogerse a un distintivo diseñado exclusivamente para nuestros productos cuando hablamos de producción

específica milenaria de producir elaborar y transformar los productos en las explotaciones agrarias generalmente pequeñas familiares en un entorno rural basada en costumbres tradicionales transmitidas de padres a hijos y que aportan una economía complementaria

cuando se comunica este decreto a la unión europea para su aprobación se comunica que dicha normativa es contraria al artículo treinta y cuatro del tratado de funcionamiento de la unión europea

a lo que la unión europea exige es verdad que todo este trámite se podía haber hecho de otra manera tal vez menos

el objetivo que queríamos todos estamos incómodos con esta modificación

este decreto deriva de la ley de política agraria y alimentaria y está claro cuál es el objetivo de la ley pero es verdad que tenemos un problema

muestra escasa o nula sensibilidad ante este tipo de producciones y elaboraciones tradicionales artesanas de productos alimentarios y que este decreto debería haber ido

en defensa del producto artesanal local y hemos firmado una enmienda los grupos partido nacionalista vasco partido socialista y el grupo popular y qué décimos en esa enmienda somos posibilistas porque

anulamos el decreto eso es la nada no propone nada propone anularlo y segundo tiene un problema tiene el problema de que los productores

y entonces ya empieza a poner cuotas pero como les gusta a ustedes acotar limitar oiga por favor estamos en un mercado libre y la producción

pero es que acotar limitar se reitera usted mucho en esos términos y nos preocupa nos preocupa mucho

pues primero instamos al parlamento europeo y a la comisión europea a que reglamente la producción artesanal agroalimentaria

porque efectivamente existe un vacío y nos parece oportuno que se comunique si ese decreto probablemente hubiese estado mejor argumentado y mejor explicado la unión europea probablemente hoy no nos encontrásemos en este problema pero la realidad es que tenemos un problema qué décimos además

legales que tenga a su alcance para que la regulación de la producción alimentaria artesanal del país vasco pueda ser compatible con el artículo treinta y cuatro

de funcionamiento de la unión europea somos posibilistas no negar porque usted no da ninguna salida a este problema no da ninguna salida en su iniciativa entonces creo que

la ley de política agraria y alimentaria el objetivo y el espíritu

preservar el medio ambiente y ofrecer nuevas posibilidades de rentabilizar la producción propia de empresas familiares de pequeño formato creemos que la enmienda que hemos firmado dentro de los parámetros que tenemos y lo que podemos tener a nuestro alcance

de verdad que creemos que este es un problema que todos tenemos una sensibilidad muy especial hacia las producciones artesanales

la moción que usted plantea no da ninguna solución y creemos que la enmienda que hemos firmado

lehendakari consejeras buenos días señorías es cierto

un profundo estudio de la realidad artesanal alimentaria vasca detectando las necesidades del sector y valorando las iniciativas que pudieran redundar en incrementar el valor añadido de unos productos que eran altamente apreciados por los consumidores vascos pero también debemos de tener en cuenta un hecho que a usted parece que se le escapa y es que

no cuenta con una normativa comunitaria para su aplicación homogénea en la unión europea y que en euskadi la producción artesanal de productos agroalimentarios ha carecido de cobertura legal específica hasta que se aprobó la ley de política y alimentaria del año dos mil ocho y este es un elemento sustancial es el elemento el pilar básico de toda esta historia y el tema que hoy nos trae aquí y usted lo sabe

es verdad representa buena parte de los recursos económicos de las familias del medio rural y litoral y el decreto ciento veintiséis de julio de dos mil doce hacía determinadas adaptaciones a la normativa comunitaria pero la comunidad europea ha ido ha pedido más y el proyecto de nuevo decreto ha variado algunas disposiciones en aras del cumplimiento de esa legislación europea ser la primera comunidad autónoma que va a poner en marcha el desarrollo reglamentario de la producción artesanal pues tiene sus pro y sus contras

entre intereses de los productores las producciones artesanales vascas

es la contra lamentablemente hemos asistido en varias sesiones al tratamiento de este tema

el decreto ciento veintiséis debe respetar ese artículo treinta y cuatro del tratado de funcionamiento de la unión europea y por lo tanto se debe garantizar la libre circulación de mercancías nos guste o no nos guste o no

y estamos sometidos a la legislación europea por tanto se debe permitir el comercio intracomunitario y el acceso de operadores de otros estados miembros al régimen de calidad regulado

ya que el artículo treinta y cuatro del tratado de funcionamiento de la unión europea establece que quedarán prohibidas entre los estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente por lo tanto el hecho de pertenecer a la unión europea

pues que aquí resultan extraños en este tema es verdad resultan extraños porque estamos hablando en un mundo global de lo pequeño de lo mínimo por lo tanto

de lo que es europa por lo tanto para adecuar la producción artesanal a la legislación europea que contempla la no restricción de operar a cualquier europea se está elaborando ese proyecto de decreto

del actual decreto ciento veintiséis promoviéndose una terminología más genérica y permitiendo el uso del distintivo de calidad identificativo relativo a la artesanía alimentaria vasca a todos los operadores europeos que se sometan al régimen previsto en el decreto la directiva de servicios europea tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros estados miembros

afecta de lleno a las actividades de producción artesanal

que contravienen las pautas establecidas por la propia legislación europea

a usted le quedará igual muy bien yo sé que en el fondo además se lo cree pero realmente no conduce a nada la legislación europea

no ha lugar no se puede con la actual legislación europea no podemos ponernos una venda pensar que aquí no va a pasar nada porque entonces estaríamos engañando

un asunto como que es legal cuando sabemos de inicio que no lo va a ser y decía que su moción planteaba dos temas por un lado

pudieran utilizar el distintivo de artesanía alimentaría vasca y por otro quería

y justificaba estas dos operaciones estas dos limitaciones por la posible confusión que se pudiera generar en los consumidores al no diferenciar un producto artesanal vasco

que haya realizado un productor que no es que no pertenece al ámbito vasco sino que es

y como le decía hay que dar realidad a las cosas vivimos en el mundo que vivimos con las legislaciones que tenemos y por lo tanto usted hablaba

transaccional son puras generalidades no llevan a nada y usted sabe que eso no es cierto esta enmienda no le satisface porque no va a lo específico no va a lo concreto y usted sabe que en lo concreto no se puede entrar

que intente compatibilizar de alguna manera la legislación europea en la normativa técnica cuando llegue a acuerdos con los productores sobre las producciones artesanales usted sabe que eso es así y que no se puede ir mucho más allá porque tenemos el arco que tenemos tenemos el listón donde lo tenemos y es la legislación europea

que la enmienda cuando décimos que instamos al parlamento europeo y a la comisión europea a reglamentar la producción alimentaría artesanal vinculada a la producción y transformación de las

explotación agraria al objeto de disponer de un marco general que permita a los estados naciones y o regiones poder reglamentar sus especificidades

esta es la clave no diga que esto es una ambigüedad esta es la clave que habrá que trabajar mucho para conseguir

pues habrá que hacerlo y habrá que insistir y habrá que hacerlo con terquedad pero esta es la clave no nos engañemos no hay más intentar que europa

provenga de donde provenga y esto nos beneficia en cierta medida a la producción artesanal vasca

que el esfuerzo de explicación de ese decreto a los productores es verdad debe

y a los acuerdos que tengan que hacerse con los productores sobre todo buscando un objetivo que es el de la viabilidad de la explotación y de la producción artesanal ese es el quid de la cuestión

cómo a través de la modificación de la legislación europea que no nos impida como está haciendo ahora poner

cómo tenemos que hacerlo mientras tanto a través de esa normativa técnica trabajada intentando compatibilizar y eso es muy difícil de ponerlo negro sobre blanco y usted lo sabe

razonablemente preocupada de que las leyes se apliquen con reglamentos

pues bien uno de los temas que se desarrolló ya el año dos mil doce por el entonces gobierno socialista fue el relativo al artículo veintitrés de la producción artesanal

aunque previamente ya se informó por la ue en febrero del año pasado la comisión que es muy pesada de verdad cuando de algunas cosas se trata solicitó nuevas correcciones y siguió insistiendo en un tema que aunque nos resulte extraño a algunos enormemente extraño

de la unión europea es el artículo treinta y cuatro del tratado de funcionamiento que ya se ha citado aquí que dice que quedan prohibidas entre los estados miembros restricciones cuantitativas a la importación

porque las restricciones cuantitativas de importación son intuitivas y muy reconocibles pero las medidas de efecto equivalente

y que de los mayores casos en el tribunal de justicia europeo y que ha generado mayor jurisprudencia una de las múltiples sentencias del tribunal europeo dice que las medidas adoptadas por un estado miembro que tienen por objeto o efecto tratar de manera menos favorable a los productos

han de considerarse medidas de carácter equivalente a restricciones cuantitativas a la importación en fin

en consecuencia tener un decreto propio que diferencia el producto alimentario artesanal que en el resto de europa parece que no existe o simplemente no ha sido informada

que la comisión entiende intolerable y vulneradora del principio de restricción al mercado

egin dugu zerbait berrikuntza horren alde para seguir con la didáctica cuando un estado aprueba una declaración de origen o de calidad alimentaria en principio

las indicaciones de origen o marcas de calidad pueden ser aceptables a partir de la reglamentación comunitaria que los aprueba solo si el producto de que se trate posee realmente cualidades y características debidas

o si el origen indica un lugar especial en la tradición de la región sería el caso de nuestras denominaciones de origen el vino de rioja

todos ellos están avalados por la normativa europea y consecuentemente por su autorización

tipo de producción que casi seguro se da en la práctica totalidad de las regiones europeas de un modo o de otro hori dela eta gure zuzenketa europako parlamentuari

frisian merkeago eta azkarrago egingo luke en cualquier caso no debe preocuparle a nadie lo ciertamente extraño del decreto y menos al señor lazarobaster y al ces que tienen realizado una alarmante lectura el mismo sí es cierto en conclusión

que quieran distinguir su producción pero no deja de ser un artilugio normativo

realmente si el productor de frisia se acerca aquí a solicitar la acreditación como productor artesano costaría otorgarle tal calificación en tanto en euskadi

ya se encargarían los holandeses de avisarnos y tampoco tengo claro que al productor frisio de queso le interese

vasco es un artificio es un bucle normativo que permite solventar la falta de norma comunitaria para pareciendo que se abre a todas las producciones europeas no terminar por producir ningún efecto anormal

autor de los cuentos de canterbury ya dijo aquello de la vida tan corta la artesanía tanto tiempo por aprender para ir finalizando

a la comisión europea se ha obrado con absoluta corrección

el tratado de funcionamiento nos obliga a poder teóricamente recepcionar solicitudes de letonia de suecia de irlanda o de frisia la realidad es que sin imaginar mucho tengo para mí que por la complejidad y las dificultades técnicas no van a venir lituanos muniqueses ni frisios a que les califiquemos sus productos como artesanos vascos

esperemos y en cualquier caso que el gobierno nos lo vaya contando alegia bide berri bat gure nekazari eta

son pequeños productores en el sentido categórico de la locución es decir pequeños burgueses tan pequeños burgueses que no les gusta que otros pueblos europeos

por un lado por qué el tres y no el cinco o el seis por otro dónde está la solidaridad entre pueblos o es solo con algunos de los pueblos de todas las maneras cuando eso ocurra lo del tres por ciento no yo que ya soy mayor usted que es más joven estará ya jubilado

también solicita establecer cupos de producción artesanal para preservar el concepto como si la denominación artesano encerrase secretamente un modo de hacer poco pues mire todo depende de lo que se trabaja un artesano que curre mucho hará más artesanía

su nuevo modelo económico al menos para el sector primario se basa en el cupo en la cuota como concepto y eso por una parte se me hace antiguo y por la otra discriminatorio con el sector primario por qué tanta cupología en agricultura y no en la fabricación de coches o de barcos todo eso suena cada vez más rancio tanto bolivarismo o agrarismo de cuota y cupo más que baserritarras siguen ustedes llenando euskadi de activos y más que de baserris